la reforma laboral del dos mil doce descentraliza los ámbitos de negociación en el sentido

uno de los cambios relevantes de la ley tres barra dos mil doce se refiere a la aplicación

ahora el transcurso del tiempo generará un vacío normativa que habrá de cubrirse por el convenio colectivo de ámbito estatal o de sector que pueda ser aplicable en la empresa si es que este existe

y no renegociados salvo pacto en contrario frente a la duración indefinida anterior

para facilitar a las empresas alternativas a la destrucción del empleo pero la entrada en vigor de la ultra actividad se produce se va a producir sin embargo en un marco en el que no se ha dejado de destruir todavía empleo

momento de la presentación de la reforma laboral por la ministra de empleo se manifestó que esta reforma estaría creando empleo antes de un año pues bien esto no se ha cumplido y es preocupante los socialistas tenemos interpuesto recurso de inconstitucionalidad en lo referente también a la ultractividad de los convenios colectivos y además

los socialistas vascos consideramos que es un error que en estos momentos en los momentos más duros de la crisis entre en vigor una medida de este calado a partir del siete de julio del dos mil trece ya veremos qué consecuencias realmente traerá esta reforma una vez que entre a aplicarse

pues puede retraer aún más el consumo en nuestro país todo está interrelacionado entre sí a contestaciones a dos preguntas que nos ha realizado el gobierno vasco

habrá finalizado el plazo legal de ultractividad en nuestra comunidad autónoma de un total de cuatrocientos veintinueve convenios de empresa que afectará a cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y dos trabajadores y en el ámbito de sector un total de noventa y nueve convenios

si no cambian las cosas para el ocho de julio de dos mil trece apenas el veinte por ciento de los trabajadores del sector privado en la comunidad autónoma contarán con un convenio en vigor eso hace que tenga una gran importancia que se avance dentro de nuestra comunidad en este campo y por eso le pido al señor consejero

en concienciar y ayudar en nuestra comunidad autónoma al consenso en la negociación colectiva

y representantes de los trabajadores lo contrario puede ser y tener consecuencias colaterales en la cohesión en la recaudación en el irpf en las prestaciones sociales y en el consumo y para ello

en consenso en ultractividad y en el órgano que atenderá los arbitrajes

hay que conseguir la mayor estabilidad posible de nuestra comunidad autónoma y para garantizarla

sabe señora sánchez que no me tiene que pedir que haga todo lo posible sino que sigamos haciendo

este gobierno y el partido que lo sustenta han mostrado en más de una ocasión como decía antes en diversos foros también en este parlamento su desacuerdo con los aspectos más importantes de la reforma laboral

y que respetamos la legislación vigente de tal manera que en el ámbito de nuestra capacidad de actuación venimos manteniendo reuniones bilaterales con todos y cada uno de los agentes sociales con el único objeto de llegar a acuerdos conjuntos en el ámbito de la negociación colectiva se están abordando varios temas relacionados con la negociación colectiva

además hay otros aspectos importantes en los que estamos trabajando como son la estructura de la propia negociación colectiva la inaplicación de los convenios o descuelgues

es el de mediadores mediante la voluntad y el empeño en seguir en la senda del diálogo y la negociación discreta además de propuestas con contenidos relacionados con los aspectos

entre los agentes sociales que permitan desbloquear los convenios colectivos pendientes de renovar serán las partes esto es la representación de los empresarios por un lado y la representación de los trabajadores por otro las que de forma libre y voluntaria alcancen o no estos acuerdos que nosotros consideramos muy importantes para el conjunto del tejido empresarial

pero le voy a decir más voy a decirle cuáles son nuestros criterios a fuerza de ser criticado por alguna de las partes la estabilidad de las condiciones de trabajo constituye

de la conflictividad y de la ordenación de la competencia empresarial la existencia de períodos máximos de negociación y de renovación de los convenios constituye también

razonable nos parece razonable que los convenios tengan un límite un período de vigencia pero nos parece igualmente razonable

más amplios de ultractividad que el previsto legalmente en el caso de convenios sectoriales dada precisamente la mayor dificultad y la lentitud

y en eso estamos en la búsqueda de ese plazo mayor que haga que el siete de julio estemos en una situación diferente y ello porque consideramos que una alteración inmediata y de carácter muy brusco en las condiciones de trabajo por el decaimiento masivo de los actuales convenios colectivos momento en el que estaríamos en el siete de julio repercutiría también de forma negativa en la actividad económica de este país debemos por tanto valorar todas las partes la introducción de cláusulas de garantía que limiten el efecto de la pérdida del convenio colectivo bien

diferenciando materias o bien desde una perspectiva cuantitativa insisto creemos que el acuerdo es posible y nos vamos a empeñar en buscar un suelo común

sailburu eguerdi on en esta legislatura la verdad es que hemos alcanzado un amplio consenso en esta cámara sobre la necesidad de la racionalización del sector público

sobre este tema en el parlamento es verdad que desde un punto de vista del entramado institucional y lo tienen también ustedes en el programa de gobierno como un objetivo aunque la verdad es que cuando he preguntado por escrito lo que he recibido ha sido una respuesta un tanto sobre esta cuestión pero además de todo esto dentro de la propia administración general vasca y en su propio sector público medidas que nos lleven a una mayor racionalidad en el gasto y a una mejora en el servicio y en su funcionamiento en el todavía vigente plan de innovación pública

la herramienta natural para lograr este objetivo es la tecnología que juega un papel clave

no funciona adecuadamente por qué no funciona adecuadamente porque cada vez son más complejos los servicios electrónicos que se prestan por parte del gobierno y los recursos económicos son cada vez más escasos este desde luego no es un problema

es un problema que en otras administraciones como por ejemplo la del estado es muchísimo más grave pero también lo es en nuestro caso y evidentemente esta insostenibilidad hay que buscarle una solución necesitamos una informática que vincule a todo el sector público vasco necesitamos distinguir entre lo que son las competencias de departamentales y absolutamente sectoriales

y necesitamos una cabeza única en el gobierno que piense cuáles son las prioridades en qué hay que gastar en mayor dinero en inversiones en informática y telecomunicaciones y no permitir que cada departamento vaya a su aire y sé que esta es una tarea difícil ordenar a los departamentos pero es absolutamente necesaria si queremos conseguir

por eso es por lo que le he realizado esta pregunta hoy a usted porque tengo especial interés en conocer si van a continuar ustedes con el trabajo iniciado en la pasada legislatura

que fije ese nuevo modelo de gestión de
telecomunicaciones informática y comunicaciones nada y muchas gracias eskerrik asko

efectivamente el gobierno como usted sabe

de una ponencia para la racionalización

nos hemos comprometido porque también la cámara ha pedido al gobierno que se presente una estrategia de racionalización y redimensionamiento del sector público y estamos realizando ese trabajo

en ese ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación estamos en un diseño

implantación de un modelo relativo a la planificación organización de las tecnologías de la información y comunicación renovado que busque la puesta en común fundamentalmente

del ámbito de las infraestructuras comunes ha dicho usted que hay un problema en la ordenación de la gestión de las

en un modelo y que eso es lo que queremos definir y diseñar que suponga sinergias en la prestación de los servicios que suponga también

en la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación y para eso

caminar hacia un modelo corporativo e integrador usted hablaba de la necesidad de integración pues sí

integrador que dé también eficiencia a la gestión de las tecnologías de la información comentaba su señoría que habían realizado unos trabajos

plan de innovación pública ipi y

al respecto nosotros estamos analizando esa acción suya del gobierno anterior y no va a caer en saco roto

del gobierno anterior que merecen la pena que ha habido unas actuaciones que han costado en fin un dinero muy importante

de ello no es este el objeto del debate y ese trabajo lo vamos a tener en cuenta

sobre las cuestiones que se plantean

reglamentaria nosotros preferimos en este momento diseñar

la organización y la gestión no echando en saco roto teniendo en cuenta pero

sobre algunos ámbitos como puede ser el referido a alcanzar consensos y sintonías suficientes

administración general y las redes sectoriales creo que ese es un esfuerzo que tenemos que realizar como usted ha dicho también es una labor que corresponde realizar internamente al gobierno pero también hay otro aspecto que nos plantea dudas y es el relativo a la centralización de algunas áreas o ámbitos como puede ser el desarrollo por parte de las redes sectoriales desarrollos específicos informáticos por parte de las redes sectoriales creo que

y en conclusión estamos trabajando el trabajo realizado hasta el día de hoy tiene un valor

estamos definiendo un nuevo modelo renovado que tenga carácter integrador
y que en la línea en la que apuntaban los trabajos lo vamos a tener en cuenta creo que tiene valías pero tenemos algunas dudas que tenemos que definir nada más y muchas gracias eskerrik asko gatzagaetxebarria

a determinados sectores del gobierno que llevan muchísimos años casi desde que se realizó la transferencia campando solos y con sus propios desarrollos

de esta tarea aunque lleve años pero merece la pena si el objetivo se consigue y creo que si no ordenamos a los departamentos de poco va a servir lo que ustedes hagan y sobre todo es importante no es una cabezonería personal hay que fijarlo en una norma porque existe un decreto del año mil novecientos noventa y seis que ni siquiera

estrictamente ahora mismo por todos los departamentos y por lo tanto si no se deroga ese decreto con un decreto nuevo que fije ese nuevo modelo de gestión van ustedes a

además si se organiza bien y se centraliza bien y se piensa bien se podría alcanzar hasta la fusión

que son las redes de telecomunicaciones y de la empresa gie que es la suministradora de los servicios de informática al gobierno por lo tanto ahí se pueden encontrar también sinergias por no hablar

este es un tema que no es novedoso tampoco en este parlamento que son las sociedades o los entes en los que participa el gobierno vasco

social y que durante muchos años y hasta la fecha de hoy

se han considerado sociedades privadas digo entre comillas porque ninguna administración tenía más del cincuenta por ciento y por lo tanto no sujetas ni siquiera al control mínimo ni de los parlamentos en este caso del parlamento autonómico ni de las juntas generales ni de los ayuntamientos que participaban en esas entidades hace un año aprobamos después de muchos años de estar detrás de este tema de cómo se podía controlar de alguna forma las participadas que algunas son

o como puede ser el propio consorcio de transportes hay muchas más salían más de cincuenta en su momento en el último listado de sociedades participadas por el gobierno y demás administraciones públicas que teníamos como le digo hace un año aprobamos una ley

en la que se decía que el gobierno vasco en este caso la comunidad autónoma la administración general promoverá la celebración de convenios con las administraciones que participan en estas sociedades mayoritariamente de capital público o mayoritariamente subvencionadas con dinero público

ese convenio se acuerde el régimen económico financiero de las mismas y por lo menos exista ese control que todavía a día de hoy no hace tanto hemos recibido en este parlamento una respuesta del gobierno sobre uno de estos entes en concreto sobre el bec sobre si se puede recibir una información o no porque como es una entidad privada

y es evidente que no se puede considerar bajo ningún punto de vista y el señor consejero que ha sido parlamentario en este parlamento conoce el tema porque lo ha llevado usted también perfectamente yo no se lo voy a explicar pero hace un año aprobamos una ley que exigía que las administraciones firmaran y digo bien exigía que firmaran un convenio porque se decía en el punto segundo

de euskadi sea igual o superior al de cada una de las demás administraciones participes

o participación del sector público por lo tanto en esta ley lo que estábamos diciendo es que si alguien quiere seguir recibiendo dinero público evidentemente tiene que haber este tipo de convenios y

sé que se pasó el verano se pasaron las elecciones sé que no ha habido mucho tiempo para hacer muchas cosas

está como debería de estar pero la pregunta que nosotros le hacemos es en qué fase se encuentran estos convenios que tenía que firmar el gobierno vasco con las demás administraciones públicas y que tienen que regular el régimen económico financiero de todas estas entidades sociedades y de más organismos en los que participamos
con más del cincuenta por ciento de las administraciones públicas eskerrik asko damborenea jauna jaurlaritzaren ordezkaria gatzagaetxebarria zurea da hitza

señor damborenea efectivamente la ley seis barra dos mil doce

una modificación horizontal de lo que es la espina dorsal de nuestro sistema de la hacienda general modifica la ley del tribunal de cuentas modifica la ley de los principios

de control económico como su señoría apuntaba las sociedades de capital o las instituciones

mayoría en sus órganos de administración en el caso de

solía originar un problema a efectos del control económico financiero no del control económico del tribunal de cuentas porque al ser sector público

pero es cierto que respecto al régimen de control económico en cuanto a su conformación interna había esa problemática bueno como usted ha apuntado efectivamente

aprobada por unanimidad pretende establecer el régimen económico financiero de las sociedades de capital con participación mayoritaria pública también de aquellas fundaciones y consorcios en las que no hay capital pero hay

que no siendo ni sociedades de capital ni siendo instituciones que

si se financian mayoritariamente por parte de las administraciones públicas

había que delimitar en estos casos el régimen económico financiero y se establecía el plazo de un año para que el gobierno propusiera a las demás

la suscripción de un convenio siempre que el régimen económico financiero no estuviera detallado el plazo de un año se ha cumplido el

nosotros no nos encontrábamos con ninguna actuación desarrollada o prevista a realizar en esta materia

asumió la responsabilidad y hemos abordado esta cuestión que como

hemos detectado ya todas las sociedades de capital y de más entidades no de capital pero sí de financiación mayoritaria de las administraciones que estarían afectadas por la ley llegaría al rededor de en estos momentos setenta y uno entidades de capital y de no de capital y

hemos empezado es a elaborar una propuesta de convenio que tendremos que plantearlos a los mismos esa propuesta de convenio puede articularse a través de una relación bilateral o también pude articularse a través de la inserción del régimen económico financiero en las entidades en las que no lo estén en sus estatutos en esa fase estamos en este momento muchas gracias señora

bueno muchas gracias señor consejero y por la respuesta que nos ha dado y si ya tienen detectadas todas las que son o las que ustedes creen que son yo lo único que me queda pedirle es

a la mayor brevedad posible el listado de todos esos entes y sociales muchas gracias

así lo haremos señor damborenea se lo remitiremos el listado a la cámara sabe usted que en principio se remitió con

documento catorce del expediente no codificado pero sí que forma parte de la documentación preceptiva del proyecto de ley de presupuestos y así lo haremos y en este momento solamente le comento que hay dos que tienen ya una regulación que son la fundación cultural dos mil dieciséis que ya tiene en sus estatutos regulado el régimen económico financiero y el consorcio que regula la fuente europea de neutrones por espalación

esan zenuen ciento dieciocho centros toda la concertada la pública

completamente aquilatar la muestra de la evaluación y sacar y obtener resultados de la evaluación científica lo antes posible para que aquellos que nos sucedieran pudieran operar

es más hasta su jefe de gobierno en una

y a propósito precisamente del desarrollo del euskera el euskera es nuestra responsabilidad

que nosotros tenemos muy clara y que ha de ser el punto central de las lenguas en la educación porque es lengua propia y porque solo a nosotros nos corresponde desarrollarla afirmó que el futuro requiere de una euskadi trilingüe y una euskadi trilingüe señora solo se consigue con una educación trilingüe esto es del señor urkullu por lo tanto adostasun

tiene un acuerdo suficiente para ese plan piloto de experimentación en el cual hay centros públicos y concertados tamaño grande y tamaño mediano y de todos los estratos sociales

tenemos la aspiración de que el trilingüismo sea acordado por toda esta cámara y creo que hay mimbres para conseguirlo

oiga una experimentación de tres años tres años no sé si le parece poco o mucho

experimentación y otras muchas cosas en educación sin ninguna experimentación tres años de experimentación ebaluaketa zorrotza

quién da más como órganos evaluadores que van a obtener resultados científicos y ya

señora es de nota cuando usted dice irakasleagoaren hizkuntza formakuntzari ekin zaion

dice ya esto es de nota cómo es posible que diga que no se ha tomado

con la seriedad suficiente la formación del profesorado cuando en una época de crisis seria porque el gobierno lópez pasó una crisis seria lo que se

para recursos para la formación del profesorado público era una cantidad

y usted en su intento de hacer un presupuesto afortunadamente retirado por ustedes mismos esa cantidad la ha llevado de un millón y pico

euros para la pública es decir ha sufrido la formación del profesorado de la pública

y esto no es solo terrible para el presente que nos acontece sino también marca y condiciona el futuro

semejante actuación porque diezmar es quitar uno de cada diez

es uno el que queda y nueve los que se quitan es decir que de cada diez profesores que estaban en formación

en formación en inglés o en otras lenguas se van a quedar en su declaración de intenciones solo uno en el futuro con una crisis económica nosotros hicimos diez usted va a hacer uno con una crisis económica pero claro la verdadera suspicacia llega después

cuando usted dice es que el trilingüismo suscita dudas con respecto al posible desarrollo del euskera

de qué fuente bebe de qué fuente filológica de qué evaluación científico lingüística para llegar a semejante conclusión entonces he de decirle señora uriarte que sus declaraciones aquí en este pleno el día quince podrían haber sido susceptibles de haber sido dichas por un miembro de la oposición pero nunca por un miembro del gobierno están a escasamente

de un miembro del gobierno porque usted ha de tener en cuenta que hay en este momento

el trilingüismo y que hay ciento dieciocho centros que han venido repitiendo su vocación al curso siguiente para estar en el trilingüismo

fueron frívolas escasamente responsables y desde luego acientíficas pero es más porque incluso desde su perspectiva desde la perspectiva de esa lógica que usted utiliza fíjese que

que el trilingüismo suscita dudas con respecto al posible desarrollo del euskera pero a continuación nos receta el plurilingüismo por lo tanto la tercera lengua extranjera puede estorbar al euskera pero por arte de magia dos lenguas más extranjeras

hacer un plurilingüismo sin utilización vehicular de las lenguas extranjeras mire

que la segunda lengua favorece el conocimiento de la tercera y la tercera el de la segunda porque la transferencia de contenidos

sea cual sea la lengua que se utilice por lo tanto es completamente acientífico afirmar y usted lo irá viendo a medida que obtenga los resultados científicos que el inglés estropea es justo lo contrario y el trilingüismo tiene la voluntad de afirmar el euskera

como lengua central porque el binomio euskera castellano ese sigue igual y además introducir una lengua extranjera pero el quiz de la cuestión es introducir esa lengua extranjera

usted ya nos puso una trampa de elefantes cuando afirmó que además no se podía seguir aportando la misma atribución horaria al inglés

que haya una confusión por su parte de mínimos con máximos es un poco alarmante porque lo que se produce en el plan piloto de experimentación lo que se aportan

lo que permite atribuir al euskera hasta un sesenta por ciento en cualquier centro educativo el caso y más del sesenta por ciento por tanto no se pueden confundir mínimos con máximos mire señora yo lo que le pido es lo siguiente

porque el punto fuerte es justamente llegar a todos los alumnos a todas las alumnas a todos los centros educativos independientemente de su renta

ese es el punto clave en el que yo creo que podríamos llegar a un acuerdo no solamente

con este otro lado de la cámara y creo que lo que debiéramos hacer precisamente ahora para evitar politizar las lenguas sino lo que tenemos que hacer realmente es política lingüística científica lo que tenemos

del trilingüismo yo quisiera comenzar por indicarle que nuestros propósitos no son otros que los de mejorar el programa que ustedes propusieron y lanzaron en la pasada legislatura un programa de cuyas bondades somos plenamente conscientes y cuyo objetivo teórico compartimos

la educación obligatoria una adecuada destreza lingüística no solo en las dos lenguas oficiales sino también en el inglés yo creo que ahí estamos de acuerdo

cuenta con debilidades desde su origen y es ahí precisamente donde radican nuestros propósitos y donde estamos centrando nuestros esfuerzos

y debilidades detectadas como usted ha comentado la primera carencia responde al hecho de haber puesto en marcha un marco de educación trilingüe sin un amplio acuerdo

es cierto que hay toda una serie de centros que están participando pero el hecho de que participen

requiere de un amplio consenso que es el que nosotros pretendemos alcanzar para garantizar que nuestros niños y niñas el futuro de nuestro país

que les permita defenderse en las diversas situaciones que les planteen en este mundo globalizado

y sería una torpeza por nuestra parte caer en el mismo error por tanto uno de nuestros retos será conseguir un amplio consenso para el futuro modelo

hay más aspectos que nos preocupan principalmente en el tratamiento que se hace de nuestra lengua porque tal y como se ha planteado

la propia la española y la extranjera en el sistema educativo sino más bien del anhelo de imponer un modelo de igualdad de tratamiento de las lenguas sin preocuparse de la situación real de cada una de ellas aunque supongo que no es necesario explicarle el porqué de mi afirmación

del informe sobre la educación en euskadi realizado por el consejo escolar que considero pueden servir de ayuda para comprender mi razonamiento según las evaluaciones realizadas a día de hoy

continúa estando en lo que se considera un nivel inicial de euskera

en el caso de modelo b el porcentaje sube a un cuarenta y dos por ciento

y este es precisamente uno de los aspectos del programa de su programa que no se tiene en cuenta

que no podemos pasar por alto y que por supuesto nos planteamos abordar y realizar las modificaciones necesarias para mejorar asimismo consideramos que este marco experimental no se ha planteado de un modo realista es decir en la situación actual con los recursos de los que disponemos y sin pretender desmerecer el colectivo docente del sistema educativo vasco que considero excepcional resulta difícil creer en una aplicación inmediata de este modelo experimental

me explico gracias a la experiencia previa de la implantación de un sistema bilingüe disponemos hoy en día de un profesorado bilingüe en un elevado porcentaje competente en castellano y en euskera pero no podemos olvidar

por lo que resulta imprescindible incorporar la competencia lingüística en la tercera lengua y al mismo tiempo tener la capacitación pertinente para impartir

y seamos realistas señora celaá usted y yo sabemos que por muy buena voluntad y predisposición que mostremos

subsanables en un corto plazo la competencia lingüística del profesorado constituye a día de hoy uno de los principales problemas para abordar los procesos de los que estamos hablando

pondremos la voluntad y pondremos los medios pero siempre desde una perspectiva realista y con unos objetivos claros y ese es precisamente otro de los aspectos que nos preocupa ya lo expliqué en mi anterior intervención

el proyecto nos inquieta la falta de concreción en los objetivos tanto los objetivos lingüísticos a alcanzar

sobre todo en lo que respecta al euskera como los perfiles lingüísticos exigibles al profesorado o las necesidades formativas del mismo porque estaremos también de acuerdo en que no es lo mismo exigir un nivel cien uno equivalente a un advanced en inglés que exigir un bmenos dos

este es un aspecto clave que debe quedar claramente definido en el nuevo programa antes de su implantación y si su preocupación señora celaá se fundamenta en la posibilidad de que comencemos a realizar modificaciones en su programa sin realizar un análisis en profundidad

somos perfectamente conscientes de que el futuro de nuestros niños y niñas depende en gran medida de la calidad del sistema educativo de hoy y por ello

un proceso de análisis diagnóstico y reflexión precisamente este curso termina el proceso de experimentación previsto en los centros de la primera convocatoria

ello nos permitirá disponer en breve de los datos y resultados obtenidos del proceso de evaluación llevado a cabo hasta el momento

a aportar al actual proceso de reflexión y al análisis final que nos conducirá a la propuesta definitiva para ello

atendiendo entre otros aspectos a los siguientes si se produce un rendimiento similar en euskera y castellano entre los grupos experimentales y los grupos de control

si el rendimiento en las competencias no lingüísticas en el caso de la competencia matemática y competencia científica no se ve perjudicado por la introducción de una nueva lengua como lengua de enseñanza aprendizaje

identificará qué centros han participado en la experimentación no han cumplido las condiciones de la convocatoria eskerrik asko uriarte

señora uriarte me alegra pensar que podemos tener una carretera común

pensar que usted afirma en ámbito parlamentario

de abrir la caja de la basura y lanzar por ella el trilingüismo porque sería tanto como realmente perder una oportunidad extraordinaria por tanto

es fundamental porque es lo que permite hacer llegar a la ciudadanía qué proyectos se tiene hable usted sin necesidad de caer

de los cariños y de los aprecios hable usted abiertamente de trilingüismo

no nos pasa nada pero sabe usted lo que ocurre que hay una diferencia fundamental entre el trilingüismo y el plurilingüismo

podemos disponer el sistema que tenemos bilingüe y convertirlo en un sistema trinlingüe hablar de plurilingüismo es hablar de dos lenguas más porque obviamente ya le he dicho que el binomio euskera castellano

ese es indiscutible pero ahora estamos hablando de una lengua extranjera más

de diez lenguas extranjeras más mire cuando yo llegué al departamento de educación ya había experiencias en algunos centros con inglés

y en otros había con francés pero no estaba generalizado

nadie lo evaluaba qué diagnóstico se había hecho entonces para imponerlo para establecerlo ninguno por tanto hablar de plurilingüismo hoy aquí es volver de nuevo a que cada quien haga lo que quiera sin evaluar científicamente y eso nos devuelve al pasado eso es lo que no queremos lo que queremos es un trilingüismo perfeccionado perfecciónelo usted que sí

de los acuerdos no me hable de que ustedes son capaces de llegar a amplios acuerdos acuerdos de qué

lo implantamos sin acuerdo mire usted nosotros hablamos con el partido nacionalista vasco con su viceconsejera reiteradas veces hasta que como era tanto el nivel de acuerdo que tenían decidieron cortar y dijeron ya no queremos más reuniones pero nunca atacaron el trilingüismo sí que atacaron eso que ha dicho usted después que desde luego no deja de ser sorprendente oiga los objetivos del trilingüismo cómo los objetivos del trilingüismo los objetivos del trilingüismo están perfectamente

están perfectamente clarificados en el currículum perfectamente y conseguiremos saber exactamente cuales son los niveles

en el momento que termine la experimentación piloto en ese momento podremos circunscribirlo a los niveles de marco europeo de referencia para las lenguas europeas que es para adultos como usted sabe por otro lado también lo podremos hacer mire usted

cuando me dice es que mire usted el tratamiento de nuestra lengua no está

el del modelo b al cuarenta y dos por ciento y el a al ochenta y seis por ciento mire usted si nosotros no planteamos un trilingüismo clarísimo científico para todos

lo que vamos a lograr es que el modelo a se caiga y se precipite

consiga esos resultados pero alguien más puede dar más

si es que el euskera no se puede aprender solo en la escuela se tiene que aprender también en la calle

esa carretera común para conseguir el acuerdo en toda la cámara

una gran potencia y es que es para todos al margen de su economía

valor que puede tener nuestro sistema educativo también en lenguas señora también en lenguas por lo tanto consiga usted ese camino común y desde luego va a tener nuestra ayuda y además va a tener nuestra ayuda para conseguir el territorio común

habla usted del trilingüismo y hablamos de plurilingüismo yo creo que una cosa no quita la otra es decir

cuando hablamos de plurilingüísmo el trilingüismo está incorporado otra cosa es cómo se hace la distribución horaria qué es lo que queremos nosotros tenemos primero que garantizar el euskera y el castellano euskera ardatza y después seguimos trabajando europa nos dice

idioma oficial más dos idiomas en nuestro caso tenemos dos idiomas oficiales

entonces haremos primero apuesta que es lo que llevamos haciendo lo que llevamos trabajando con nuestros modelos lingüísticos euskera y castellano

creo que podemos seguir trabajando y creo que podemos llegar a consensos y podemos

una cuarta lengua no podemos despreciar el hecho de que haya una cuarta lengua entonces en eso también vamos a tener que trabajar esa es nuestra idea

y el hecho de que sea un trilingüismo y que pueda ser un plurilingüísmo no tenemos que desechar el que sea un y cuando hablamos de partir de situaciones tenemos que tener en cuenta cual es la situación real que tenemos no es lo mismo cuando hablamos en un centro

un centro que tiene todo un recorrido en base a los idiomas que un centro que apenas ha implantado el inglés

entonces tenemos que tener en cuenta de cual es el punto de partida a la hora de hacer

entonces hay que saber exactamente y lo que nosotros décimos utilizando

vamos a aprovecharlas vamos a utilizarla vamos a aprender y vamos a avanzar y eso es lo que pretendemos avanzar para ello décimos

esos son los que queremos queremos establecer cuales son los objetivos exactamente qué nivel queremos que tengan nuestros alumnos

qué nivel deben tener los profesores para poder dar esa enseñanza plurilingüe queremos definir cuál es el porcentaje en qué proporción tienen que darse los idiomas y no va a ser lo mismo en un centro que en otro no va a ser lo mismo en un centro que tenga el modelo quinientos que un centro que tenga el modelo a

es decir tenemos que conseguir y eso va a ser en lo que vamos a trabajar y yo creo que hay mucho en lo que podemos estar de acuerdo y en lo que estamos de acuerdo

que es más cara a la galería que cara al interior yo creo que no distamos mucho en las que hay y es por eso que nosotros sí recogemos su propuesta de trabajo y trabajaremos conjuntamente eskerrik asko

sí gracias presidenta buenos días señora consejera

una de las primeras decisiones tomadas por la directora de e i te be

ha sido cambiar el mapa del tiempo de etb quiere decir esto que para ella este asunto tiene relevancia y es ciertamente importante lo anunció el mismo día que fue nombrada por este parlamento directora del ente

su primera declaración pública su primera preocupación fue cambiar el mapa del tiempo ya digo esto

es un asunto ciertamente importante para ella posteriormente

pero lo cierto es que fue el primer anuncio que hizo la directora de e i te be

es decir cambiar el mapa del tiempo para engañar a la ciudadanía vasca utilizando la televisión pública

nacionalistas para los intereses del partido nacionalista vasco para vendernos al conjunto de los ciudadanos vascos la gran euskal herria

decisión como consejera cómo se justifica en definitiva la inclusión de territorios ajenos a la comunidad autónoma vasca en el mapa del tiempo

maneiro jauna como usted ha comentado tal vez una de las primeras acciones que tomó la directora de

pero no creo que fuera su primera preocupación sino que fue en respuesta a una demanda bastante intensa que estaba recibiendo por otro lado en la justificación previa a su pregunta afirma usted que la nueva dirección a parte de cambiar en el cambio del mapa

meteorológicas en los servicios informativos de euskal telebista se incluyen bajo unas mismas delimitaciones geográficas la comunidad autónoma del país vasco

pues bien si lo que usted quiere decir es que el mapa del tiempo de etb quedan reflejadas de forma clara las diferentes realidades administrativas compartimos lo que dice pero si de su enunciado quiere sugerir con la expresión incluir

no es cierto las demarcaciones administrativas de la comunidad autónoma vasca son precisas y claras en el actual mapa del tiempo

así pues consideramos que figura claramente la comunidad autónoma vasca donde se incluye los territorios históricos para facilitar la interpretación de poblaciones y clima

al distrito administrativo de baiona y por último figura claramente la comunidad foral de navarra aunque en este caso no se han introducido sus merindades y comarcas maneiro jauna

esa es una realidad pero existe también otra realidad que no podemos obviar cuál es el área de referencia de e i te be cuál es el espacio de comunicación de e i te be la propia ley de creación establece que la misión de e i te be como apoyo al euskara y la propia cultura en este sentido en el devenir de estos treinta años

también en navarra y en el país vasco francés así mismo existe una extensa infraestructura de distribución de la señal de radio y televisión de acuerdos institucionales

que comprende la comunidad autónoma vasca la comunidad foral de navarra y el país vasco francés

en el espacio cultural y territorial que cubre el mapa de euskera

yo no sé si este asunto era la máxima preocupación de la nueva directora de e i te be pero ya le digo que sus primeras declaraciones giraron entorno a este asunto

claramente nacionalista por eso tomo esta decisión por eso esta fue la primera decisión que tomó y por eso intuyo que para ella este asunto es de gran relevancia

inaceptable que se utilice la e i te be para producir ciudadanos nacionalistas que es lo que se ha hecho históricamente en euskadi decía usted que es una demanda que

qué demanda a qué demanda se refiere usted yo en todo caso le digo y pienso que el mapa del tiempo debe reflejar la realidad institucional vasca no el proyecto de la gran euskal herria que nos quieren vender los nacionalistas esto es lo que tiene que reflejar el mapa del tiempo

políticos con el objetivo de defender un determinado proyecto político somos los vascos los que pagamos los impuestos de e i te be y por lo tanto el mapa del tiempo de etb

a la realidad institucional vasca cualquier otro objetivo

no es sino la pretensión de defender el gran cuento chino nacionalista es decir la gran euskal herria el objetivo es decir vendernos la mentira de que vascos navarros y franceses del sur formamos parte de una misma comunidad

que se busca ese es el objetivo que se intentó lograr en el pasado durante largos años y este es el objetivo que la nueva dirección del ente y este gobierno

ya para finalizar no vamos a entrar en discusiones si de las declaraciones

qué provienen si provienen en contestación a una pregunta pero bueno no va a ningún sitio

es evidente que la comunicación y sus elementos narrativos precisan de coherencia

pero que ni etb ni el departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco los considera ajenos por los motivos expuestos y en mi opinión tanto los vascos de la comunidad autónoma como los navarros y los de iparralde
formamos parte de una misma cultura la vasca eskerrik asko uriarte

consejera recientemente la viceconsejera de educación arantza aurrekoetxea hizo unas declaraciones relacionadas con las políticas educativas del departamento entre otras cosas se señalaba textualmente que el gobierno está trabajando en una propuesta de revisión de los modelos lingüísticos dirigida a que los alumnos mejoren sus competencias en euskera

obligatoria vaya por delante que nos parece bien que se intente por supuesto mejorar las competencias lingüísticas en euskera y también en castellano de los alumnos vascos nos parece un propósito correcto se dice que en el modelo a los niños no alcanzan el suficiente conocimiento de euskera pero no se explica en qué va a consistir esa revisión del sistema de modelos recogido

qué otras repercusiones importantes puede tener esta previsible modificación de los modelos lingüísticos por eso yo le pregunto aunque sé que en una pregunta oral tampoco se pueden decir demasiadas cosas

del sistema de modelos lingüísticos recogidos en la actual ley que anuncia el gobierno vasco a través de las declaraciones de la viceconsejera gracias

es cierto será necesario modificar la formulación horaria del modelo a si se quiere conseguir dicha condición

ya que el sistema actual basado exclusivamente en el castellano no es válido para garantizar un conocimiento práctico de las lenguas oficiales ni mucho menos para conseguir una sociedad

explicación luego puede seguir explicándolo en todo caso sí que quiero decir también desde esta tribuna que el objeto del sistema educativo

el objetivo del sistema educativo es formar a los alumnos pero en fin

también le he dicho en mi primer turno que efectivamente está bien tratar de mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes de los alumnos es correcto

puedan tener conocimientos suficientes en euskera también es un buen

las siguientes preguntas se garantizará en el futuro el derecho de los alumnos a seguir estudiando en castellano se garantizará lingüística podrá seguir siendo el castellano lengua vehicular para todos aquellos que así lo deseen existirá esa opción

efectivamente así nos parece absolutamente fundamental garantizar este derecho que el castellano pueda ser también lengua vehicular

se va a garantizar esto o no le escuchamos atentamente eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko uriarte andreak dauka hitza

en contestación concreta a sus preguntas esta revisión de los modelos lingüísticos

el conseguir realmente que nuestros alumnos y alumnas tengan un conocimiento tanto de castellano como de euskera y que puedan desarrollar perfectamente sus capacidades lingüísticas y luego como hemos comentado anteriormente introducir la tercera incluso la cuarta lengua es decir queremos alumnos plurilingües

modificar lo que son la dedicación horaria dentro de los modelos por lo tanto no quiere decir que vaya a desaparecer el castellano como lengua vehicular

de elección por parte de las familias de cuál es el modelo lingüístico

sí gracias buenos días nuevamente señor consejero el pasado día veintiocho de febrero el pleno del parlamento vasco rechazó una iniciativa de upyd que pretendía instar al banco de españa y a las entidades financieras

y fagor a reembolsar de modo inmediato aquellos consumidores con un perfil de riesgo conservador

del capital invertido consumidores con un perfil de riesgo conservador son aquellos que no tienen experiencia inversora previa no tienen cultura financiera

suficiente en el asunto en su lugar se aprobó lo que puede denominarse como una enmienda estafa digamos una enmienda transaccional acordada entre el grupo nacionalistas vascos y eh bildu que instaba a kontsumobide

en este asunto si la información ofrecida fue suficientemente concreta y clara si pudo inducirlos a confusión y si puede considerarse engañosa y por otro lado a intervenir de oficio en los conflictos producidos entre los clientes que hayan adquirido activos financieros de riesgo o productos financieros similares y las entidades financieras impresas que los hayan comercializado o emitido

teniendo en consideración las propuestas de las partes ya digo una enmienda estafa

y eroski y que no tenía otro propósito que salvar la cara

ese era el objetivo fundamental de esa enmienda transaccional firmada por el partido nacionalista vasco y por eh bildu

en las últimas semanas una enmienda estafa en la que ni siquiera se nombraba

y que tenía como propósito básico el de salvar la cara determinados intereses

dado que el instituto no puede obligar a ninguna entidad a devolver el dinero

mientras tanto la directora de kontsumobide prejuzga en una entrevista reciente que eroski y fagor lo hicieron bien y eso nadie lo puede negar decía además de afirmar que la mayoría de entidades financieras que comercializaron los productos financieros ni contestan

que kontsumobide ha perdido la imparcialidad imprescindible para arbitrar las reclamaciones que presenten los consumidores afectados

por una de las partes generando una desconfianza evidente sobre su labor arbitral o mediadora que se convierte a día de hoy en irrelevante dos meses después de la aprobación de aquella iniciativa y a la vista de que el problema no tiene visos de solución

su opinión sobre los pasos que se han dado así como sobre los pasos que se van a dar en el futuro inmediato y sobre su opinión acerca de si el camino que hemos transitado durante estos dos meses puede dar mucho más de sí dado que los afectados reclaman y esperan una solución no humo reclaman una solución

en lugar de venderles humo que es lo que se ha hecho durante estos dos meses

parece una evidente comercialización fraudulenta

e interpelarle a usted para que explique los pasos que se han dado en los últimos meses para solucionar lo que upyd considera un fraude y una estafa

en nuestra opinión por parte de las entidades financieras que las comercializaron a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros suficientes a quienes se les ofreció una información insuficiente tergiversada manipulada incompleta y engañosa

vienen denunciando por todo ello le interpelamos sobre posibles soluciones a dar a los afectados gracias eskerrik asko maneiro jauna

en primer lugar y volviendo a lo que esta mañana he contestado al señor barrio del partido popular

son las personas las que preocupan a kontsumobide no deja de dejarme sin palabras el que una persona de su responsabilidad desde esta tribuna utilice la terminología que usa en algo que de momento

que tenga el carácter de una estafa pero bueno cada uno es responsable de sus palabras

se ocupa de formar a las personas para que conozcan sus derechos y obligaciones porque también tenemos que preocuparnos de saber hasta dónde llega nuestros derechos

y usuarios se preocupa también de que las empresas entidades y profesionales conozcan y cumplan sus obligaciones cuando venden sus productos

a disposición de las personas consumidoras y usuarias y cómo no también de intentar resolver los conflictos que surgen entre las partes en materia de consumo los datos que hasta ahora

demuestra su eficacia en la labor de mediación en los conflictos que afectan a los consumidores

tiene como resultado la satisfacción de las demandas y la resolución de las reclamaciones de las personas que solicitan la mediación en la justificación de su interpelación que usted también ha leído de aquí desde la tribuna señor maneiro afirma que kontsumobide ha prejuzgado y que ha perdido la imparcialidad para arbitrar las reclamaciones que los consumidores presentan en este caso

ha tomado partida por una de las partes debo decirle que estoy en total desacuerdo sigo creyendo en la labor de kontsumobide y en sus profesionales que lo componen en mi opinión

y eficaz en materia de conflictos y confío plenamente en que sigan desarrollándola de aquí en adelante pese a sus palabras de desánimo no lo dude también quiero decirle que afirmar como ha dicho usted y como podemos leer en el texto que ha presentado que las aportaciones financieras de eroski

son una evidente comercialización fraudulenta es un claro ejercicio de lo que supone un prejuicio irresponsable

hablar con esa ligereza de fraude y estafa desde la posición que usted ocupa

y no conceder a una de las partes ni siquiera el beneficio de la duda berriro esango dizut hasieran esan dizudana

sí gracias presidenta en nuestra opinión ha habido

estafa es nuestra opinión estafa no una sino tres tres estafas evidentes primera estafa la comercialización fraudulenta de las aportaciones financieras subordinadas

por parte de determinadas entidades financieras estafa una información no transmitida omitida

manipulada o corregida en el momento en que se pretendía colocar a los distintos clientes de las entidades financieras es decir a los que decidieron adquirir este producto aconsejados obviamente por trabajadores de las entidades financieras esto se llama estafa engañar a los ahorradores

legal pero comercializado de manera fraudulenta colocado a personas con las que existía un alto grado de confianza

se dejaron asesorar por quien se suponía podían confiar siendo engañadas obviamente esto se llama fraude y se llama estafa no se les informó adecuadamente de que se encontraban ante un producto de alto riesgo

transmitiéndoles una información sesgada incompleta o manipulada se les engañó y esto se llama estafa hay miles de ciudadanos vascos

la primera estafa en nuestra opinión evidente hay una segunda estafa

que es la transaccional firmada por eh bildu y por el partido nacionalista vasco el pasado día veintiocho de febrero y que no tenía otro objetivo que proteger los de determinadas personas para dejar de lado los intereses de aquellos ciudadanos que habían sido engañados esa es la segunda estafa la estafa política en forma de transaccional firmada por el partido nacionalista vasco y eh bildu

más que para defender los intereses del grupo mondragón esto se llama tal como estamos pudiendo comprobar en los últimos tiempos nosotros tomamos partido

por los ciudadanos que han sido engañados a los que se les ha engañado a los que se les ha mentido a los que se les ha manipulado

por esos ciudadanos y hay una tercera estafa que es kontsumobide en este caso

por las personas sino todo lo contrario tal como usted decía

no estápreocupada por las personas sino por defender determinados

y afiliada del pnv se permite el lujo de tomar partido y defender

por lo que la supuesta labor de kontsumobide que debía realizar queda absolutamente anulada esta es por lo tanto la tercera estafa nosotros pedimos que la señora

dimita o sea cesada por sus declaraciones y por el trabajo no realizado en los últimos dos meses pedimos que dimita o que

para volver a traer este asunto al parlamento vamos a instar

las aportaciones financieras de eroski y fagor a rembolsar de forma inmediata el cien por ciento del capital invertido a aquellos consumidores con un perfil de riesgo

insuficiente tendenciosa incompleta o engañosa vamos a volver a traer este asunto al parlamento en forma de moción y vamos a plantear este asunto y vamos a pedir también en esa moción la dimisión de la directora de kontsumobide por haber tomado partido por una de las partes

y veremos qué grupos políticos se mojan qué grupos políticos defienden a los ciudadanos estafados y qué grupos políticos defienden otro tipo de intereses

sí señora presidenta por alusiones del señor maneiro al grupo parlamentario y tal y como dice el reglamento quisiera pedir la palabra baina badakizu aluzioetan bakarrik sartu zaitezkela ante las alusiones que

quisiera aclarar que la voluntad del partido nacionalista vasco en todo momento ha sido la defensa de los intereses

que se haga referencia a que este grupo parlamentario ha estafado a nadie

jarraitu dezagun obviamente tendré que responder yo

zurea da hitza kontsumobide está buscando soluciones a cada una de las reclamaciones
que ha recibido y créame que cada una

las conculcaciones de los derechos de los consumidores se han podido dar o no en cada caso concreto cada reclamación tiene su pretensión y cada caso tendrá su respuesta a cada una de ellas kontsumobide le está dando un tratamiento particular

ni en el caso que nos ocupa ni en el resto de casos que atiende kontsumobide pero créanme los únicos

son la imparcialidad y el afán de velar por los intereses de las personas consumidoras y usuarias como usted bien conoce

si una de las partes no la acepta así que tengo que recordarle que esta cámara pidió hace dos meses que se estudiara y analizara cómo se habían llevado a cabo esas transacciones si se habían hecho o no bien las cosas pero en ningún caso el arbitraje y eso es lo que estamos realizando

estoy pensando qué puedo decir o qué no puedo decir voy a intentar ser lo máximo correcta posible señor consejero

y a su directora a su gobierno hechos son razones señor consejero no

nosotros los socialistas también confiamos en los trabajadores de kontsumobide y estaría bien que les preguntasen su opinión a cerca de las declaraciones que ha hecho su directora

en calidad de directora de kontsumobide en torno a las participaciones subordinadas de eroski y fagor cualquier responsabilidad de estas empresas asumiendo que ni las empresas ni las entidades bancarias están obligadas a aceptar las soluciones que se les pudiera proponer cuestionando las salidas que ya han asumido otras entidades financieras que habían optado por este sistema e incluso las decisiones judiciales en fase de recurso y poniendo en duda la actitud de las personas que adquirieron dichas participaciones

y son estas declaraciones señor consejero las que motivan esta interpelación las declaraciones unas declaraciones poco apropiadas unas declaraciones

para arbitrar una solución digna a las subordinadas fagor y eroski unas declaraciones que han propiciado

ante la nula confianza que les inspira el instituto en la defensa de sus derechos ante sus reclamaciones porque señor consejero

ya se ha posicionado acudiría usted a kontsumobide buscando mediación si el árbitro ya ha tomado partido por la otra parte

comparecieron el veinticinco de febrero en la comisión de salud y consumo y nos contaron que habían adquirido estos productos financieros de riesgo con información engañosa lo contaron ellos y lo hicieron confiando en que este parlamento arbitrara una solución digna a su problema

su dinero y la respuesta de esta cámara se sustanció en el pleno del veintiocho de febrero donde los grupos nacionalistas vascos y eh bildu unieron sus votos para qué

quien intervenga de oficio para resolver en los conflictos producidos entre los clientes que hayan adquirido activos financieros de riesgo las entidades financieras que las han comercializado y las empresas que las han emitido

y para encontrar soluciones a las reclamaciones de devolución

las propuestas de las partes y cómo ha respondido kontsumobide posicionándose claramente por las empresas emisoras y por las entidades comercializadoras y cuestionando

el motivo de esta interpelación no es prejuzgar ni a las empresas que emitieron las subordinadas ni a las entidades que las comercializaron el grupo socialista ya hizo el debate el veintiocho de febrero en esta cámara y presentó su propuesta y con qué nos encontramos pues con la alianza de nacionalistas vascos y eh bildu que optaron

los socialistas nos mantenemos firmes en lo que dijimos el veintiocho de febrero que la mediación es insuficiente y por eso tenemos que agradecer a la directora de kontsumobide

comprobamos que teníamos razón y que el acuerdo de este parlamento queda invalidado precisamente por sus palabras

esto no lo digo yo no lo décimos los socialistas vascos lo dicen con rotundidad los afectados y la asociación de magistrados y jueces para la democracia señor consejero

sean los de avalar la legalidad de la práctica de venta de subordinadas y salvaguardar el honor de las empresas como si alguien aquí en algún momento hubiera querido atacar a las cooperativas aludidas y nos preocupa e inquieta

si ha podido haber un abuso de confianza un aprovechamiento un posible engaño

y por la relación de proximidad entre un agente bancario y un cliente este haya sido perjudicado por mucho que la letra de la ley lo permitiera y señor consejero

haya hecho dejación absoluta de su responsabilidad porque kontsumobide no se creó para cuestionar a las personas y defender a las empresas o a las entidades financieras se creó para defender y preservar los derechos de las personas consumidoras y usuarias

este gobierno y todos los gobiernos están en la obligación de definir planificar impulsar y ejecutar políticas en materia de defensa y protección de las personas sí de las personas consumidoras y usuarias

cree usted que la señora greaves que mezcla de manera desordenada las acciones de su amama con estos productos comercializados como depósitos garantizados está legitimada para seguir al frente del instituto

yo desde luego no me siento capaz de determinar las razones que movieron a todas y cada una de las personas que adquirieron esas participaciones no sé si muchas o pocas buscaban una alta rentabilidad de sus ahorros y conocían el riesgo lo que sí sé

que dicen que desconocían el riesgo que dejaron ahí parte de su esfuerzo de años

y cuando han necesitado su dinero cuando han querido recuperar su dinero no lo han podido hacer tal y como se les había informado sin embargo la directora de kontsumobide

las participaciones subordinadas sobre hábitos de ahorro si no lo ha hecho cómo puede poner la carga de pruebas sobre los afectados

y que tiene sus ahorros en estas participaciones no podría acceder a la renta de garantía de ingresos por el supuesto valor que tienen y que si lo recupera perdería parte de los mismos sabe la señora greaves que existen ciudadanos que deben de atender algunas urgencias derivadas de la crisis

sabe que hay entidades que precisamente por la presión social y la actuación de otros organismos de consumo en españa están rectificando

lo sabe usted señor consejero y lo más importante qué va a hacer va a transmitir alguna directriz al instituto de consumo va a dar cauce a las demandas de los usuarios

todos los requisitos para comercializar estos productos sobre sus riesgos y si se han dirigido a clientes con un perfil adecuado en definitiva que se dé amparo y solución a aquellas personas que hayan sido engañadas

sus ahorros por ello le pregunto cuáles son los propósitos del gobierno vasco en relación a la protección de los consumidores afectados por una adquisición de aportaciones subordinadas una vez constatada la pérdida de imparcialidad de kontsumobide en esta materia y esto señor consejero sí que es un tema de personas

supongo que como me tenía de frente usted lo habrá visto bien a mí tampoco es más

en primer lugar tengo que decirle que los trabajadores de kontsumobide su directora el consejero de salud y este gobierno están desde el principio

lo que no tenemos es una bola de cristal como parece usted tener complejo y en el que cada persona es distinta

que usted parece tener vuelvo a repetir para nosotros la imparcialidad de kontsumobide no está en tela de juicio tal y como usted afirma lo he repetido ya

no ha tomado partido por ninguna de las partes intervinientes en este conflicto y además está cumpliendo con el mandato de este parlamento como es su obligación desde que esta cámara

señora sarasua a mediar en el conflicto que no hacer de árbitro se ha trabajado y se está trabajando para dar cumplimiento a este mandato y tratar de encontrar soluciones al conflicto asimismo el objetivo de kontsumobide

en reiteradas ocasiones también en esta cámara ha sido y es comprobar si se ha vulnerado alguno de los derechos de las personas consumidoras

se ha analizado la información facilitada a las personas

en el momento de la adquisición de esteproducto financiero si fue suficiente y acorde a las características de lo que se les vendía en este sentido

en relación a las aportaciones financieras subordinadas no es otro

a susreclamaciones mediando con las entidades o empresas

afectadas señora sarasua yo creo que usted se ha adelantado y cree que el partido acaba en el minuto veinte pero no cada partido tiene su tiempo y se lo explicaremos al término kontsumobide

a este respecto en primer lugar ha intentado resolverse la información ofrecida fue suficientemente concreta y clara algo que ha kontsumobide le está constando tiempo a kontsumobide y a los profesionales que en ella trabajan

que hablen con usted que ha debido hablar con todas las personas y lo tiene absolutamente claro en segundo lugar

a las reclamaciones de devolución de la inversión de los afectados teniendo en consideración las propuestas de las partes y desde luego para que no lo duden sus señorías les vuelvo a decir que atender a las personas afectadas es lo que ha quedado de su actuación y también

mientras no esté acabado velar como no puede ser de otra forma velar por las empresas afectadas y las entidades financieras que han comercializado los productos

de cómo ha sido todo el proceso no podemos olvidar que

o al menos hasta la fecha no se ha demostrado lo contrario no podemos adoptar la postura del rey salomón cada

no hay una solución única para todos los casos y así de forma individualizada es como los profesionales

con su directora están trabajando eskerrik asko darpón jauna

a las personas yo tengo dos orejas dos oídos y una lengua para utilizar para escuchar dos veces

y hablar una y eso es lo que debiéramos de hacer todos no hablar primero y luego escuchamos y vemos

y en esta cámara se está viendo hoy con todas las interpelaciones preguntas de todos los grupos hasta los que primero se unieron con el partido que sujeta al gobierno

y no de mediación pero es que usted ha dicho que no lo tienen claro hasta que se termine el arbitraje es que yo creo que no lo tienen claro

es que la emisión de las aportaciones financieras que fue realizada por las cooperativas eroski y fagor tendría la verificación de la comisión nacional del mercado de valores y otra muy distinta es cómo se comercializaron sí cómo se comercializaron estos productos de alto riesgo financiero

caso a caso porque miles de ciudadanos se han sentido engañados porque las entidades financieras no les han dado una información certera y en muchos casos se les aseguraba que podrían recuperar su dinero a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas porque no se les advirtió de ese riesgo real ni de su perpetuidad y bajo una opaca información confiaron en su entidad de toda la vida o en aquel empleado que siempre les había atendido

el partido empieza en el minuto uno pero es que mucha gente ya está fuera del tiempo

cuando su directora les ha señalado directamente a ellos como culpables en junio de dos mil doce el tribunal de justicia de la unión europea estableció una doctrina que debe estar presente

esta sentencia referida a las cláusulas abusivas en un contrato hipotecario resolvía precisamente una cuestión que está en el fondo del caso que estamos hablando establece que aunque la legislación nacional establezca determinadas condiciones a las que se pueden acoger las prestaciones de servicios y las firmas de contratos en la defensa de los consumidores debe prevalecer la directiva europea del año mil novecientos noventa y tres y según esa directiva

para proteger al consumidor hay sentencias judiciales en españa en donde los jueces que no pueden por sí anular las cláusulas previstas en las leyes nacionales sí pueden acogerse a esta doctrina

decidió introducir un nuevo artículo en el código civil para dar potestad a los secretarios judiciales para determinar la condición abusiva de alguna cláusula a los socialistas

de las personas consumidores y usuarias lo sorprendente es que la directora de kontsumobide no sea conocedora de estas situaciones que quien tiene que proteger a los consumidores no haga valer la doctrina europea y se pliegue a la legislación nacional cuando esta favorece los intereses de las empresas

nos parece que desde las instituciones debiéramos emprender una acción global en esta materia que los ciudadanos

por las actuaciones que podamos emprender porque en estos tiempos de crisis hay algunas empresas que intentan suplir carencia de negocio con recovecos legales que compensen

jurídica y viabilidad de dichas empresas es proteger a los ciudadanos

vemos que los jueces han empezado a adoptar una posición activa en esta materia las demás instituciones no podemos descargar la responsabilidad y el trabajo en los tribunales tenemos que asumir la nuestra señor consejero tenemos que actuar y necesitamos que el gobierno vasco también lo haga que atienda con rigor a las situaciones de desprotección en la que se quedan los particulares kontsumobide

las sistematiza y una vez al año presenta un informe con las quejas debe ser un instrumento de defensa y protección

al gobierno no hemos venido a hablar de las empresas que emitieron o comercializaron participaciones subordinadas hemos venido a exigir que los ciudadanos que se sintieron engañados puedan recuperar el dinero que les prometieron que podían recuperar y estaría bien que kontsumobide les ayudará en lugar de limitarse a levantar la acta de queja

está haciendo su trabajo vamos a esperar a que lo termine la imparcialidad

señora sarasua los ciudadanos continúan recurriendo a kontsumobide a cursar sus reclamaciones y a obtener información

a riesgo de aburrirles la prioridad de kontsumobide es resolver de forma

individual cada una de las reclamaciones y dar respuesta a las pretensiones

le aseguro que están trabajando en esta línea me alegro por la segunda respuesta que me ha dado que al menos le haya quedado claro que hay que estudiar caso a caso porque en la primera intervención

las empresas emisoras y las entidades financieras comercializadoras para dar soluciones satisfactorias lo antes posible todavía

siguen llegando reclamaciones de las personas afectadas señora sarasua están llegando una media de catorce reclamaciones por día esta semana también

en total tenemos por el momento trescientos dieciséis reclamaciones porque queremos buscar la solución para las personas afectadas y este es nuestro cometido y no otro apelamos también a la responsabilidad de todos y todas con el fin de que podamos resolver este conflicto y dar satisfacción a las partes berriro ere esan behar dut ez dute uste

ya es la tercera interpelación de hoy sobre el asunto de las aportaciones subordinadas de eroski y fagor y desde euskal herria bildu

con alegría como otros grupos se suman a las soluciones que hemos planteado esta semana en este caso upyd

que mantiene y respeta y directamente asume uno de los puntos

como resolución del problema de las aportaciones

que estafar es apropiarse de las soluciones que aportan otros al problema para hacerlas suyas y defender que son suyas pero bueno no voy a entrar en las valoraciones que otros pueden hacer sobre lo que hemos propuesto

y tampoco vamos a entrar sobre lo que pueda ser moralmente o legalmente el problema

pero visto lo visto tanto parece ser que por el señor darpón el debate fue un debate vacío el gobierno no ha asumido lo que se decidió el gobierno hace oídos sordos

aceptaron el grupo nacionalistas vascos conjuntamente con euskal herria bildu y ustedes están haciendo de lo que podían ser unas soluciones están haciendo realmente un problema es que no se está respetando lo que se ha decidido

se está mostrando una prepotencia ante los y las afectadas esa es la única respuesta que se está dando desde este gobierno a lo que

estafa financiera orquestada por que también hay que decirlo porque aquí se nos olvida decir quiénes han orquestado esta estafa

banco santander y acompañada por las demás entidades financieras comercializadoras que son banco popular con sentencia en firme bbk

caja laboral etcétera etcétera etcétera pero hay que decirlas todas todas un problema al que desde el poder judicial

sentencias que dejan a las claras que evidentemente esas personas han sido estafadas y encima lo han sido por las entidades financieras con las que han mantenido

diferenciaba entre los afectados de galicia por las preferentes y los afectados vascos

pero no solo vemos cómo se descalifica a los y las afectadas desde la misma dirección de kontsumobide vemos cómo esa institución pública sirve de escudo para las entidades financieras

al colectivo de afectados ustedes debían mediar no lo hicieron qué papel tiene kontsumobide qué están haciendo ha acudido

ustedes debían aportar principios de evaluación para la definición de los afectados como tal no lo han hecho

cómo están resolviendo el problema en qué se está avanzando en el caso de que hayan sido las propias entidades financieras

al llamamiento de kontsumobide y de esta cámara cómo se atreven ustedes a cuestionar en ese caso a los afectados poniendo la prueba de la falta en los que se declaran afectados y no en las entidades financieras

y es posiblemente la que menos me gusta los debes en el balance financiero

que ponen por delante de los intereses de la ciudadanía los intereses económicos ustedes no quieren una solución buscaban dormir el problema acallarlo han escondido la cabeza ya que lo que no se ve no existe

misma semana hemos pedido la rectificación pública de belén greaves

o en caso de no producirse exigimos su dimisión tiene fecha esa rectificación pública

rectificación pública el pasado veintisiete de marzo pedimos su comparecencia en comisión

usted no ha venido a comparecer en comisión en más de un mes con un tema que claramente se está enquistando a nivel social y así lo muestran los medios de comunicación y que por lo menos deberían poner

nada hemos recibido en dos meses de ustedes pero no podemos exigirles nada más allá de lo que queda en esta cámara sin embargo los afectados sí pueden exigirles y responsabilizarles de bloquear la situación ellos tienen la legitimidad plena para darles a ustedes un baño de realidad

ustedes defienden los privilegios de las entidades financieras euskal herria bildu no elige entre unos y otros ya que estamos hablando de clase trabajadora vasca unos representados como trabajadores y otros como ahorradores ambos pueden verse perjudicados por este problema de la subordinadas

flaco favor les están haciendo además ustedes defienden los derechos de las entidades comercializadoras y los mayores responsables de ellas que son bbva y banco santander y eso lo han dejado claro con la postura de kontsumobide el veintiocho de febrero acordamos en pleno

euskal herria bildu entendía que era necesario la participación de kontsumobide como mediador y árbitro

se llegó hasta mediador un ente público debería ser encargado de hacerlo

pues está claro que cualquier opción fuera del departamento de sanidad y consumo que usted dirige ya que belén greaves es a la mediación lo que estados unidos al conflicto de palestina

se ha hecho hasta el día de hoy está claro que el gobierno ha errado pero puede dignificar a su departamento haciendo autocrítica y reorientando la actuación autocrítica pública e inmediata háganlo y háganlo cuanto antes euskal herria bildu ha hecho pública una de las soluciones que podrían desbloquear la actual mediación

en su departamento ni en el gobierno y mucho menos en kontsumobide

escuchen y lleguemos a soluciones conjuntas y compartidas y devolvamos la confianza a la ciudadanía

del dinero a los y las afectadas a los y las estafadas

hay que conseguir la nulidad de esos contratos y que las entidades financieras tengan que sentarse a negociar y dar soluciones a lo que ha sido una de las mayores estafas que ha sufrido este país

en el pleno del día veintiocho de febrero y el periodo de kontsumobide ha pasado

pero lo que es momento de buscar son soluciones porque de lo que estamos hablando son de los ahorros

tocar su dinero ni buscar soluciones ya que este gobierno no le da ninguna eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jaurlaritzaren

es con prepotencia téngalo absolutamente claro

seguramente las declaraciones no fueron excesivamente afortunadas ahora el problema de kontsumobide

aquí la proposición no de ley que ustedes firmaron junto con nuestro grupo se la voy a leer

que hayan adquirido activos financieros de riesgo o productos financieros similares y las entidades financieras y empresas que los hayan comercializado o emitido si la información ofrecida fue suficientemente concreta y clara

también se instala el instituto vasco de consumo a que intervenga de oficio en los conflictos producidos

o productos financieros similares y las entidades financieras y empresas

o emitido al objeto de encontrar soluciones

soluciones a las reclamaciones de devolución de la inversión de los afectados teniendo en consideración las propuestas de las partes

y sobre todo en aras a cumplir las funciones propias de kontsumobide se ha analizado la problemática general a través de contactos mantenidos con

emisoras las asociaciones de consumidores y con la denominada asociación de afectados el mes pasado se puso a disposición de las personas adquirientes

el formulario de reclamación tanto en la página web como en sus servicios territoriales

también señor lópez de munain me gustaría recordarle que este gobierno vasco

en las oficinas municipales de atención al consumidor y en las asociaciones de consumidores

de recabar toda la información necesaria para dar una respuesta a las personas afectadas

de los derechos de las personas consumidoras como se afirmó en su momento

varias veces a lo largo de esta sesión como medida concreta de análisis de la situación el pasado nueve de abril se puso a disposición de las personas que han considerado sus derechos como consumidores vulnerados

que a día de hoy se ha rellenado por trescientos dieciséis usuarios es decir como he dicho anteriormente una media de catorce reclamaciones por día el objetivo principal del formulario es analizar

si la información ofrecida fue suficientemente concreta o clara

inducía a confusión o a fraude se lo voy a repetir el objetivo del formulario es

y clara nosotros no prejuzgamos estamos dejando trabajar a las personas

estamos dejando hacerles su trabajo confiamos

además hemos solicitado a las entidades financieras que vendieron las aportaciones a las personas consumidoras

que ejecutaron fraude la documentación relativa al número de clientes de cada entidad que han suscrito aportaciones financieras de cualquiera de las dos cooperativas los importes totales comercializados y su distribución por omisiones

porque nosotros no estamos prejuzgando a día de hoy kontsumobide también ha requerido a estas entidades el modelo del test

los folletos informativos los de publicidad

y los criterios seguidos para la perfilación de los clientes que han suscrito las aportaciones como ve

están trabajando en cada caso sin prejuzgar la primera conclusión que se obtiene del análisis de los datos es que el motivo principal de las reclamaciones es

sobre la característica del producto financiero a perpetuidad lo llamado a perpetuidad que tienen estas aportaciones financieras subordinadas ustedes acusan al gobierno de mostrar voluntad para solucionar

creo señoría que lo que he explicado desmonta esa afirmación institutuaren eta gobernuaren borondatea legebiltzarreko agindua

lo primero es agradecer que por lo menos el consejero diga que las declaraciones en este caso de la directora de kontsumobide no han sido afortunadas por lo menos

cuanto más le escucho más preguntas me genera

tanto los afectados como las entidades comercializadoras quiénes

todas las entidades comercializadoras han acudido solo algunas

dentro de kontsumobide para buscar una solución

y de nombres también yo creo que es importante sobre todo para que la opinión pública también

una forma de solución otra pregunta que me gustaría hacerle es si usted ha tenido siempre toda esta información que ahora nos está dando por qué no ha comparecido en comisión se lo pedimos hace más de un mes usted no ha tenido la voluntad de hacerlo es ahora cuando vuelve a salir

cuando vuelve a estar en la agenda pública cuando usted viene aquí a dar explicaciones pero porque se lo pedimos no porque usted tenga ninguna voluntad de hacerlo

como posible solución para desbloquear la situación en la que se encuentra ahora el problema de las subordinadas

que eran bien claras son cinco puntos claros por un lado exigir la prohibición ha usted se le ha olvidado también comentar que el primero de los puntos era la eliminación

iba a tener la voluntad política de eliminar este tipo de productos financieros de alto riesgo

tampoco se está haciendo creo por otro lado que se pongan los medios necesarios para

y nosotros como alternativa y nosotras proponíamos también que podría ser incluso en los colegios de abogados ya que kontsumobide por lo que se ve desde las organizaciones de afectados en este caso

por otro lado devolver el dinero de la estafa y luego que esas entidades financieras

en este caso con las cooperativas para dar una solución al problema que venía

de ese producto cuarto rectificación pública

cuanto antes sino ya hemos dicho que exigiremos su dimisión quinta su comparecencia en comisión

ustedes que son el gobierno no nos pida a los demás ni haga uso

que nosotros asumimos con el papel que firmamos el día veintiocho y con cada uno de los puntos y así lo hicimos y así lo hemos hecho ustedes no han cumplido

el gobierno no ha cumplido pero no ha cumplido ni con nosotros ni con el grupo de nacionalistas vascos y es que directamente

que decía claramente usted está defendiendo

su imparcialidad pero que con frases como esta directamente ya deja claro cuál es su posición y es que una directora

diga frases como el cliente debe probar que no le dieron las explicaciones adecuadas y que le hicieron pensar que el producto era fácilmente liquidable

yo cero que no eh yo cero que es la entidad financiera la entidad comercializadora

lo contrario y es que finalmente

existe un problema pero de fondo y es la actitud del gobierno ante la ciudadanía y cómo responde este gobierno a los y las afectadas por una estafa financiera y no está dando ni la altura ni tienen ustedes la altura de miras

contundente y completa a este problema eskerrik asko eskerrik asko

pero no tenga usted duda yo no me voy a encontrar escondido seguramente nunca

y créamelo es porque estábamos esperando a tener todavía más resultados

es porque unas declaraciones en el periódico no muy afortunadas no porque hayan insistido

eso es lo que ha motivado la presencia de todos los grupos lo demás estaríamos trabajando en lo que nos debíamos que es las personas de kontsumobide

de acuerdo a la proposición no de ley que nos encomendó este parlamento en su interpelación me pregunta por las líneas de trabajo que ha sido el gobierno bien le diré

ha mantenido contactos con eroski con el bbva con el banco de santander

con el banco popular con caja laboral con la caixa y con el banco de sabadell y con bankia desde el día ocho de febrero y lo sigue manteniendo en la actualidad además ha mantenido contactos con adicae euskadi

y con las tres organizaciones de consumidores con las que tienen firmados convenios de colaboración

y veinte de marzo y siguen trabajando con cada una de las personas que han puesto una reclamación

se desprende que lo último que está haciendo este gobierno es evadir su responsabilidad

nos preocupan las personas que han reclamado nos preocupa que no les estafen lo que no hemos hecho es prejuzgar todavía

el resto de empresas implicadas tanto las entidades financieras como las cooperativas pero no estamos prejuzgando que lo hayan hecho bien no estamos buscando el resultado este tipo de afirmaciones

el objetivo de infundir temor y desconfianza en las personas que han adquirido estos productos que ya de por sí tienen bastante hace dos meses nos

que estamos dando por lo tanto entendemos que lo que corresponde

y esperar a tener los resultados herritarren lasaitasunagatik erantzukizunagatik

gracias señora presidenta buenos días a todos señora consejera este tema

este grupo le hizo una pregunta relativa a una inversión tan importante para bilbao para bizkaia como es la línea tres del metro es cierto que esta línea como le dije no era la línea por la que apostaba el partido popular al principio nosotros apostabamos por una línea que uniese

para que apesar de no ser la línea elegida por este grupo no apostemos

de la misma como le dije en ese momento cuando se presentó

que en este año ya estaría acabada pero los vecinos en este año zanjas y obras están viendo muchas pero bocas de metro no van a ver ninguna posteriormente se ha datado en el dos mil catorce

y mucho nos tememos que parece que esta infraestructura puede sufrir más retrasos y además ha sido además de esos retrasos objeto de críticas de problemas de cambios y de aumento de presupuesto una inversión que ha tenido una desviación que ronda

que requiere una explicación de una desviación tan importante como le dije también se ha unido el cambio de gestor los cambios de su diseño el intento de automatizar el trazado y además ha sido un tema que como tantos otros

responsables gubernamentales nacionalistas y socialistas se tiraran los trastos a la cabeza y se los siguen tirando porque cuando uno pregunta a la diputación se responsabiliza al gobierno vasco socialista de que no daba información de que no informaba de la realidad económica de la obra de que no se sabía cuál era la situación real

era necesario arreglar los temas de colaboración con la administración involucrada y lo cierto es que según hemos tenido conocimiento de los doscientos setenta y siete millónes que tiene previsto la obra solo cien están ejecutados y esto va a suponer que

de los barrios bilbaínos de txurdinaga otxarkoaga zurbaranbarri y uribarri van a tener que seguir esperando

disminución de plazas de aparcamiento que han venido sufriendo estos años incluso algunos

y algunos comercios han tenido que cerrar según ellos por el efecto cárcel que les supone las obras y es más incluso hace pocos días una ambulancia tuvo problemas para acceder

consecuencia de que las obras le impedían el paso trastornos e incomodidades que han soportado con la vista puesta en el final de las obras y que evidentemente se van a ver

sufren más retrasos y la verdad es que nosotros le hicimos la pregunta porque lejos de la importancia que para este

porque cuando el lehendakari presentó los presupuestos citó expresamente como una de las

de las infraestructuras que iban a ser reorganizadas y reprogramadas la línea tres del metro es cierto que luego después el señor bilbao después de reunirse con el señor

y que el señor azkuna también dijo que la apuesta seguía vigente pero con cambios técnicos pero lo cierto es que se paró hubo momentos en los que estaba parada y que después está ralentizada y que ahora parece que no son muchos los obreros que están en esta construcción pues bien yo le hice la pregunta

en qué consistían esas decisiones tan importantes y yo se lo dije en ese momento creo que ni sí ni no sino todo lo contrario no nos aclaró nada no nos dijo qué significaba reprogramar reorientar y

supone ir más allá de ese horizonte de dos mil quince la verdad es que fruto de la incapacidad del gobierno

para esta infraestructura va a ser la misma que la del año anterior puesto que los presupuestos del dos mil doce están prorrogados

ustedes siguen con esa reordenación esa idea de reorganización de replanteamiento van a

ejecutar toda la partida que está prevista o esa reorganización y reordenación va a significar que no se va a ejecutar porque se van a producir retrasos

esos retrasos se van a dar que lo comentase responsables de euskal trenbide sarea señalaron que

y señalaban cuestión importante esta que con más recursos económicos se podría ir más rápido pues bien

tenemos ahora una oportunidad de tener más recursos sabemos que la unión europea ha relajado el cumplimiento de déficit público para españa en dos años más

sobre cómo redundará una ampliación de este plazo en el déficit de las comunidades autónomas lo que sí sabemos como le decía es que en todas las comunidades autónomas

pero insisto todas vamos a tener mayores fórmulas de financiación y todas

que ocasionan las inversiones publicas es más el señor lehendakari hoy aquí ha dado una cifra exacta aunque nosotros

no nos atrevíamos a dar una cifra exacta el señor lehendakari sí la ha dado ha dicho que serían doscientos cuarenta y cinco millónes por ello desde este grupo

queremos interpelarle para que manifieste un compromiso público para que de esa más que posible cantidad excedentaria de recursos se destine parcialmente a la financiación de la línea tres del metro una parte que una parte

que el destino de esa posibilidad suplementaria de financiación es una cuestión política es cuestión de prioridades es una cuestión como le digo de voluntad política de apuesta estratégica de su gobierno el destinarlo a una cuestión o a otra cuestión y desde este grupo

que la línea tres del metro es una prioridad para su gobierno como lo es para este grupo un compromiso claro nítido inequívoco que no albergue dudas respecto como le decía de que entre las prioridades del gobierno del señor urkullu está la línea tres del metro porque la línea tres del metro supone mucho más que un simple ramal de suburbano supone un elemento vertebrador de bilbao

supone conectar determinados barrios de bilbao históricamente desatendidos para conectarlos con el centro de la villa y con el resto del territorio histórico supone tejer no solo físicamente sino también socialmente a través de una red de transporte

las principales ciudades europeas disponen de redes de metro muy amplias

a los parámetros de las principales plazas europeas la ampliación del metro se antoja como imprescindible si queremos ser punteros y ofrecer una imagen de modernidad

más retrasos y dilaciones en el tiempo como le decía tenemos una nueva oportunidad tenemos

no existía sobre la mesa una posibilidad suplementaria de conseguir

pues bien para este grupo como le digo la línea tres del metro es una prioridad queremos saber si para su gobierno también nada más muchas gracias eskerrik asko

naiz intentaré ser clara lo más clara y precisa posible y

tampoco en juicios de valor con algunas cuestiones porque esta historia es ya muy antigua

cuando nosotros hablamos en el contexto de la elaboración de los presupuestos hablamos de reprogramación reordenación

nos referíamos a que había que ver cómo afrontábamos esta obra porque nos parece prioritaria nos parece fundamental y además

las lógicas molestias de las obras en marcha a la ciudadanía

la abordamos pero qué nos encontramos nos encontramos

que contemplaba ciento cincuenta y tres millónes de euros una serie de cambios en el proyecto de ampliaciones de revisiones de precios una serie de cuestiones

pues prácticamente cien millónes más y nos encontramos con que no había acuerdo

con la otra institución que estaba cofinanciando la obra de ahí que entendiéramos

por el principio por mantener y por concertar con las administraciones implicadas todos esos créditos necesarios y suplementarios sin entrar a valorar por qué

pero eran documentos aprobados y

por tanto nos encontramos un convenio del dos mil ocho con diputación foral de bizkaia de ciento cincuenta y tres millónes de euros

hasta casi los doscientos setenta millónes de euros ampliaciones modificaciones insisto la actualización de precios suponía un treinta y ocho por ciento

es un importe grande también las aportaciones

y ha habido algunas cuestiones como

que supuso una ampliación de presupuesto también

algunas afecciones la modificación del cañón de zurbaranbarri definido después de la firma del convenio todas estas son las cuestiones que están en el expediente y están

el año pasado se ejecutaron veinticuatro millónes de euros en presupuestos de este año

gobierno vasco y eusko trenbide sarea estamos todavía cerrando los cuadros de financiación acompasando la capacidad de inversión de cada una de las instituciones

es un ejercicio que no se hace de la noche a la mañana y cada uno tenemos

problemas presupuestarios y estamos viendo de la mejor manera

el año pasado veinticuatro millónes para este año con la prórroga veintitrés mantenemos habíamos puesto veintitrés en el proyecto de presupuestos perdón y lo mantenemos en la prórroga

señora llanos le diré alto y claro que a pesar de que a mí no me guste llega hasta el dos mil diecisiete

la puesta en servicio con todo con el mobiliario con la señalización con todo efectivamente estoy de acuerdo con usted en que la posibilidad de incorporar créditos que en este momento podemos ver podemos debatir con las diputaciones desde luego la apuesta del gobierno será que parte de esos créditos extraordinarios que podamos tener vayan a esta obra

tampoco se puede correr todo lo que uno quiere a pesar de tener todo el dinero que uno quiere en el punto en el que estamos

pero en cualquier caso insisto estamos barajando unos cuadros que nos llevan hasta el dos mil diecisiete

para el dos mil quince porque también estamos jugando aquí con fondos europeos que nos obligan a terminar algunas de las actuaciones

gracias de nuevo señora presidenta y gracias señora consejera porque

en algunas cuestiones ha sido más precisa que lo fue cuando le hicimos la pregunta yo realmente

se anunció en el dos mil nueve esta obra realmente se dijo que se iba a tardar tres años

pero claro de tres años a que van a ser

la verdad es que es muchísimo tiempo yo comprendo que pueden surgir imprevistos que pueden surgir problemas en el trazado pero

me cuesta creer que son solamente imprevistos físicos creo que ha sido

que como en muchísimas cosas que afectaban al metro ha habido un problema de comunicación un problema

entre la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco anterior que creo que nos han llevado a la situación que está actual más allá

es previsible que puedan llegar a surgir que evidentemente son cuestiones que no se pueden tener previstas de inicio que puedan surgir pero un retraso desde el dos mil doce que estaba previsto que se iba a finalizar hasta de cinco años perdón que antes he dicho diez de cinco años que se va a

de esto esperemos que ahora se resuelvan sí que es cierto usted ha dicho que están a la espera de la firma del convenio no sabemos en qué fecha se va a producir no sabemos cuáles son exactamente las dificultades porque lo cierto es que ahora partidos políticos responsables de ambas instituciones son los mismos con lo cual creo que en ese sentido quiero entender que facilitará más

para la firma de este convenio y para empezar a poner plazos yo me alegro que usted diga

que es una infraestructura por la que apuesta yo se lo decía en mi primera intervención yo creo

de evolución y de innovación y además usted que también es consejera de medio ambiente seguro que apuesta de forma decidida por el transporte público y sostenible

por el transporte público y sostenible no puede ser un eslogan que todos digamos en campaña electoral o cuando estamos anunciando determinadas infraestructuras y después no se cumplan si realmente queremos tener un transporte público y sostenible hay que apostar

que invertir o emplear dinero en inversiones supone invertir en piedras no poner dinero en inversiones y ponerlo en la línea tres del metro supone invertir en personas supone invertir primero en todos aquellos a las que se les va a dar empleo gracias a que van a trabajar en esta infraestructura

que van a poder estar mejor comunicados gracias a esta línea tres del metro luego apostar por inversiones el que el dinero público vaya a inversiones no significa poner como dicen algunos de protagonistas

también protagonistas de la acción pública a las personas y yo le decía tenemos esa posibilidad de mayor financiación la tiene el gobierno vasco y la tienen también las diputaciones porque el propio señor urkullu de esa posibilidad de ir más allá dijo que se iba a compartir con las diputaciones luego se trata de aunar voluntades políticas de que todos apostemos por ello y yo creo que aquí usted tiene y con este proyecto

de que realmente este gobierno apuesta por una infraestructura como el metro

sobretodo por el bien de infraestructura que lo tenga y sobretodo esperamos que realmente de esa prueba del algodón

salga absolutamente usted con el algodón limpio y absolutamente

bien efectivamente no solo había la revisión de precios que hemos comentado antes había

el convenio insisto estaba entre dos instituciones cerrado a ciento cincuenta y tres millónes de euros y después una de las instituciones aprueba estas mejoras y estas desviaciones da por buenas y en el banquillo digamos entonces falta por atar todo eso cómo se hace frente a esas mejoras a esas ampliaciones y demás

en ese cuadro corregido estamos yo he estado revisando a raíz de su interpelación y de las diez o doce preguntas por escrito que me ha hecho ya esta cámara sobre la línea tres

algún responsable que me precedió habló de que bueno pues que en dos mil dieciséis ya veríamos si todo iba bien y tal nosotros

absolutamente serio comprometido y llega como le he dicho con total claridad también llega

nuestra apuesta por el transporte sostenible es clara evidentemente sabemos que eso necesita inversiones y también necesita más cosas necesita cambios de hábito necesita cambios de hábito en la ciudadanía y en todos nosotros porque

los modos sostenibles de transporte siguen sin tener

el atractivo suficiente para los ciudadanos y creo que esa es una reflexión que nos conviene hacer a todos

y de movilidad sostenible y que implicarán a todas las administraciones de la comunidad autónoma

por esta obra e intentaremos

y esperamos salir bien parados de la prueba del algodón señora llanos eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako

en los cuarenta años conforme al más estricto respeto al derecho internacional y de acuerdo con la doctrina consolidada de la onu

no es legal y que no tuvo ni puede tener efectos jurídicos o políticos

así mismo consciente de la responsabilidad histórica legal y política que el estado español

tiene con la situación en el sahara occidental hace un llamamiento al gobierno de españa para que

como único y legítimo representante del pueblo saharaui

exige al reino de marruecos el escrupuloso respeto a los derechos humanos en el territorio ocupado

y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui aktiboki lan egin dezala europar batasunaren barruan minus hori